gracias señor lehendakari buenos días señores consejeros señora consejera señorías

que hemos mantenido para este pleno fundamentalmente me referiré a

trascendentes en el sentido de que habla de la técnica legislativa utilizada por el gobierno que se viene repitiendo de una manera ciertamente constante vamos a votar a favor del proyecto de ley tal y como se ha presentado pero sí nos gustaría señor consejero

a nuestro juicio nos parece como una técnica legislativa equivocada y me explico muy brevemente

se hace obligatoria expresamente además así se dice la cesión el suministro de datos de datos personales que afectan a la intimidad de las personas orientación sexual religiosa

esos datos protegidos por la constitución expresamente protegidos de una manera especialmente protegidos pero en el artículo cuatro punto tres esa obligatoriedad se remite o se condiciona al consentimiento expreso de la persona que remite esos datos hay cierta contradicción en la técnica legislativa y por eso hemos enmendado

ese apartado pero además de esa contradicción señor consejero señorías

recordar que la ley estadística del país vasco que es una

que las leyes posteriores en este caso esta deben de tener en cuenta o en cualquier caso no debería de corregir como fórmula legislativa todos sabemos que una ley posterior

pero no como técnica legislativa habitual no es lo adecuado pero a lo que voy

el consentimiento expreso en la cesión de datos que afectan a la intimidad

expreso el consentimiento en cambio

de la ley que hoy votamos no lo contempla así no exige el cumplimiento expreso por lo tanto aunque puede hacerlo

más adecuada es decir excepciona la ley que hoy votamos la ley marco suprime

de la ley estadística por lo tanto no tiene sentido como regla general señor consejero que allí donde la ley marco esa

sea exceptuado esta obligación del consentimiento expreso de una manera puntual por leyes como esta que son con una vigencia limitada una vigencia acotada y que son leyes puntuales en ese sentido también y sentencias del tribunal constitucional hay numerosas

la cesión de datos sensibles y estamos hablando de cesión de datos sensibles

por lo tanto a la intimidad de las personas deben de ser siempre proporcionados y deben de ser siempre

como es la que hoy planteamos y no se acompaña en esta ley la suficiente a nuestro juicio la suficiente justificación en la manera de

de datos por lo tanto este es el sentido de las enmiendas que hemos presentado por eso las hemos mantenido porque no nos parece suficientemente bien

la técnica legislativa empleada y nos parece una materia suficientemente sensible

bai eskerrik asko presidente andrea señor sémper no le entiendo

el texto cuyo apartado pretendía suprimir es exactamente el mismo texto

en vigor actualmente y que ustedes votaron a favor en la época en la que gobernaba el gobierno socialista y no entiendo cuál es el cambio de criterio el cambio de opinión

además la comisión jurídica asesora de euskadi admite la validez

recabados tratados y cedidos los datos incluidos en este artículo cuando por razones de interés general

no creo que no haya ningún impedimento legal en meter esto en la ley y en recabar por parte de la población este tipo de información por otra parte también habían propuesto creo que no lo ha mencionado no ha entrado en detalle

pide propone salvar la temporalidad de la disposición incluyéndola en una ley

es la ley oportuna para meterla en este mismo sentido se expresa la agencia vasca de protección de datos y estimamos que la utilización de registros administrativos y registros de aquellas empresas actividades reguladas y controladas por el gobierno son básicas para evitar molestias a los informantes y además reduce enormemente el coste de las operaciones estadísticas por lo tanto no vamos a poder admitir

de escaño muy brevemente efectivamente tiene usted razón

que se convierta en técnica legislativa la modificación de una ley marco o de los principios generales que establece una ley marco es lo que nos parece un error por lo tanto

un plan puntual que sometía a consideración de esta cámara o que aprobó en esos términos la reacción de la ley por eso lo votamos a favor cuando vemos que se repite como técnica legislativa es por lo cual llamamos la atención que nos parece un error es decir estamos hablando

que afectan a la intimidad de las personas el legislador nosotros debemos de estar a la altura en el tratamiento de esa información

establece una serie de requisitos establece una serie de condiciones muy expresas

en la cesión de datos sensibles creemos que leyes puntuales que tiene una vigencia acotada en el tiempo como es la actual

y creemos que tal y como está planteado el texto que hoy sometemos a votación no se recoge de esa manera

apunta y que es cierto porque votamos a favor de este mismo texto en el anterior plan tenía su justificación le insito y perdón porque me repita porque no era una práctica habitual

con otro plan puntual con una vigencia temporal muy acotada que modifica o que no recoge de manera expresa lo que la norma general dice

mantenemos las enmiendas pero vamos a votar insisto a favor del texto planteado muchas gracias eskerrik asko sémper jauna erantzuteko

que da continuidad a los seis planes anteriores en materia estadística se han expuesto ya los objetivos y características y hoy hay que seguir reivindicando la importancia de este sistema de estadísticas fiables probablemente es difícil que se entienda la utilidad práctica para el ciudadano de esta ley pero gracias a ella y a esa fiabilidad

se puede no solo aproximarse a la realidad socioeconómica sino que permite planificar la acción política y tomar decisiones que sí son de utilidad por eso

precisamente acercarnos aún más a la sociedad que los datos sean recogidos bajo criterios de independencia profesional más accesibles para todas las personas y sobre todo inteligibles en defensa de la transparencia en la gestión que defendemos que estén

clasificada por departamentos y en formato reutilizable en el portal open data también hemos querido que la ley recuperara la recopilación de información administrativa relativa

que parece que es un área que no suscita gran interés en este gobierno y se le había pasado por alto recopilar esa información en este tiempo de trabajo en la comisión y como suele ser habitual se han incorporado muchas de las aportaciones de cada grupo aunque se mantienen algunas enmiendas reservadas y diré que mi grupo no ha compartido las reservadas por el partido popular ni tampoco los argumentos dados

con respecto a las de eh bildu nos hemos opuesto porque están basadas en un criterio de territorialidad que entiendo que reivindiquen pero

está en vigor en la número cuarenta y nueve sobre la estructura de explotaciones agrarias eliminaba la referencia a euskadi como el ámbito sobre el que se definen esas políticas

intencionalidad con la que lo justifican y que a nosotros desde luego se nos escapa lo mismo ocurre con las referidas a la recogida de información de las cuatro diputaciones forales y del territorio del euskera en cualquier caso aprobamos hoy una ley para los cuatro próximos años

para más concreción exactamente la segunda ley traída por este gobierno al parlamento la que hoy avalamos era una de las herencias que había dejado el anterior gobierno socialista

es de dos leyes aprobadas a iniciativa del gobierno y una parte de presupuestos no existe en la historia de euskadi un balance similar y la iniciativa legislativa sigue de la mano de los grupos parlamentarios recuerdo que dos leyes a instancias del grupo socialista

otra de mano de los socialistas y pnv con la aceptación de plazos en la ley del suelo

y bueno entiendo que antes de que acabe el año se puede aprobar otra conjunta de socialistas y nacionalistas sobre el instituto de la memoria y la ley de vivienda traída por los
socialistas está apurando ya sus trabajos y hay otras tres abiertas a iniciativa de los ciudadanos sarasua andrea explicación de voto da termino diciendo que nosotros respaldamos esta ley

y sobre quien reside la responsabilidad de poner sobre la mesa proyectos eskerrik asko eskerrik asko zuri gai zerrendako bigarren puntua mozioa

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos dice

en la justificación de su iniciativa que los recortes en las ayudas a los medios de comunicación en euskera no son aceptables y son injustificables y dice que los medios de comunicación en euskera sean escritos audiovisuales o de internet

y dice también que más allá de ser agentes fundamentales para la normalización del euskera los medios de comunicación en euskera son herramientas imprescindibles

imprescindibles para la normalización del euskera e independientemente de su contenido de su función social o de su difusión o alcance es decir que son imprescindibles absolutamente por el simple hecho de que se realicen en euskera ninguna otra variable tendría por lo tanto mayor relevancia en conclusión según el señor isasi todo el dinero que se dedique a ello

aportarles más conociendo al señor isasi y su trayectoria parlamentaria solo espero que nunca llegue a ser consejero de nada

y cultura al lado suyo en fin el señor bastarrika sería un moderado a partir de ahí presenta sus propuestas

que en caso de no cubrir las necesidades de los medios de comunicación en euskera posibilitar el uso de las ayudas asignadas a la promoción del euskera en medios de comunicación en castellano

o en su totalidad para satisfacer las necesidades de los medios de comunicación en euskera y supongo que si ni así llegaran las ayudas

y nuestros propios ahorros para la consecución de tal fin sin nosotros yo creo que lo único que se busca con esta iniciativa por lo tanto es aumentar las ayudas a berria y al resto de medios editados en euskera

comunidad con fuerte diglosia apoye la educación y la expansión de la lengua minoritaria y por lo tanto las publicaciones en esa lengua minoritaria apoyadas por los poderes públicos esto se lleva haciendo desde siempre en euskadi pero todo tiene unos límites y además estamos en una sociedad

de forma artificial aun asumiendo que pueden tener un soporte económico de las ayudas públicas en nuestra opinión deben ser rentables también

de la rentabilidad lo que no es de recibo en nuestra opinión es que dependan exclusivamente de las ayudas públicas

y sus anunciantes tendrán que replantearse el negocio si no consiguen más lectores puede que sea no solo porque se edite en una lengua determinada sino también

por sus contenidos o por su ideología y también esto evidentemente estos medios de comunicación tendrían que analizarlo muy seriamente en estos tiempos

las redes sociales y las nuevas tecnologías hay decenas de medios de comunicación que están haciendo recortes

que cerrar en todos los sitios del mundo y en todos los idiomas del mundo es una consecuencia de la crisis y de los cambios y lógicamente esto también afecta a los medios que se editan en euskera

el futuro e impulsar también cambios internos para poder ser sostenibles y no únicamente confiar en las ayudas públicas lo que no se puede exigir es que sean

por otro lado es curioso que en estos momentos de crisis y de recortes sociales en un momento donde se han recortado las subvenciones y ayudas a todo el mundo lo único que le preocupa al señor isasi sean los medios de comunicación

en el tiempo que lleva en esta cámara y su obsesión en nuestra opinión los medios en euskera reciben cantidades muy importantes incluso

que pida que si no llegan las subvenciones con las partidas de euskera que se quite los medios en castellano para pasárselas a los euskaldunes esto

no ha sido incluida en la transaccional que ustedes han firmado es así ustedes han firmado una transaccional que saldrá adelante nosotros no vamos a apoyarla nosotros vamos a votar o votaríamos aunque finalmente no se va a votar porque va a salir esta en todo caso la defenderemos la enmienda que nosotros hemos presentado

a mantener una política lingüística no discriminadora exenta de abusos

de la comunidad autónoma vasca el parlamento vasco considera planteamos que los medios de comunicación para ser realmente objetivos y libres y esto es muy importante

empresas competitivas y no depender exclusivamente de las subvenciones públicas para su supervivencia efectivamente esta enmienda no se llegará
saldrá aprobada la que ustedes han firmado nosotros no vamos a apoyarla y por lo tanto mantenemos nuestra enmienda de totalidad y nuestros argumentos gracias eskerrik asko

para empezar quiero agradecer algo que no suele ser frecuente en esta cámara y yo me incluyo el señor isasi se ha referido personalmente a mí para agradecer el trabajo realizado en esta transacción no tenía por qué hacerlo

y yo mismo hemos hecho un esfuerzo grande por alcanzar una transacción

aunque no sea un punto cuantitativamente importante porque es un punto que afecta a la política lingüística y aquí entramos de lleno en el tema yo me siento muy contento de la transacción porque entra de lleno en lo que los socialistas estamos trabajando con intensidad y sinceramente que es mantener en lo posible los acuerdos políticos y sociales respecto

durante treinta y cinco años a donde estamos que es en un avance importante y por lo tanto al lado de la promoción del euskera

eso no significa que cualquier desmán que se pudiera producir que cualquier gasto excesivo o injustificado en la coyuntura que vivimos

eso significa que si hay un desmán lo denunciaremos que si hay un gasto excesivo no estaremos de acuerdo pero sí que analizaremos cualquier propuesta o haremos cualquier iniciativa

en el caso que nos trae hoy aquí se ha planteado un conflicto que yo creo que hay que centrar un conflicto porque ha habido una modificación en una

para aquellos medios de comunicación que utilizan el euskera en todo o en parte y lo que se venía haciendo durante años se ha modificado

la convocatoria del año pasado de tal manera que sin que haya incremento de dinero como se ha dicho

una reordenación de los criterios y por lo tanto de las subvenciones para casos concretos y eso ha afectado principalmente a aquellos medios que son diarios y que publican íntegramente en euskera y que además

todos los territorios del euskera todos los posibles lectores en euskera y en eso estamos centrados el gobierno ha creído conveniente reorganizar los criterios que ha explicado el viceconsejero la convocatoria y creemos que el resultado

porque ha provocado que en el caso de berria que se ha citado una disminución de doscientos ocho mil euros

en la subvención que ha recibido este año para su funcionamiento pero hay algún otro caso otro concreto que ha disminuido también por ver la resolución por ejemplo euskara

ha tenido una reducción también del veinte por ciento la de berria se acerca al catorce por ciento es verdad que las cuantías no son las mismas

no voy a decir aquellos que han aumentado es lo mismo se ha producido una reorganización y creemos que el gobierno tiene que revisarlo yo me alegro que

necesidad de analizar con

cuál es el criterio más adecuado para que en el futuro sea sostenible sobre todo y en esto se centra la transacción que hemos alcanzado

con una particularidad aquellos medios de carácter general que se publican diariamente e íntegramente en euskera que se publican y los que se pudieran publicar es verdad que eso no abunda

lingüística que tenemos es la que es entonces por qué razón primero una subvención es verdad que a los medios en castellano no se les da ninguna subvención sí se les dan ayudas la publicidad institucional financia de manera importante a los medios

la que se hace con normalidad y con criterios legales que es la que se debe hacer y reciben ayudas a veces por publicidad para

proyectos concretos y eso son unos ingresos que provienen de los fondos públicos que son importantes para los medios pero no tienen los medios de comunicación en general una subvención directa y está bien que así sea

estos medios de los que hablamos hoy de comunicación no reciben una subvención por medios de comunicación sino por su contribución a los objetivos de la política lingüística y no entiendo yo por qué se cuestiona eso si no se cuestiona que en otros ámbitos en otras actuaciones en distintos sectores sociales culturales y administrativos la promoción lingüística del euskera

se financie con unos fondos que se estiman necesarios para distintos fines en ese sentido

y es que los medios de comunicación son fundamentales para la normalización lingüística

idioma pueda aprenderse si no se tiene como una parte del estímulo del aprendizaje el recurso diario a un lenguaje actual con contenidos de carácter general que pueden ser laborales que pueden ser culturales que pueden ser

otros medios que por su capacidad de difusión por su difusión territorial

a cuestiones necesariamente más locales de interés pero que no afectan a eso y no solo para el hablante no solo para el aprendizaje el hablante de una lengua tiene que tener acceso incluso para perfeccionarla a de publicaciones de carácter general por lo tanto creemos que en la revisión de la subvención debe de particularizarse de nuevo como se hacía durante muchos años dentro de los grupos en los que se subdividen los criterios de esa subvención estos

del euskera en su difusión ahora bien mejorar la convocatoria no quiere decir una carta blanca cuando se dan fondos públicos también hay que exigir un comportamiento adecuadamente correspondiente de esos medios

que acabo de expresar pero en nuestra opinión deben de considerarse algunas condiciones como que atienda

que reciba fondos públicos especialmente si el código deontológico de un periódico cualquiera de un medio de comunicación debe de incorporar ese principio los medios que reciben fondos públicos con más motivo y además debe de exigírseles por quien lo da la atención a la pluralidad de la sociedad vasca en su línea editorial en sus contenidos

dentro de la libertad lógicamente del ejercicio periodístico pero dentro

de ese marco y a la hora de conceder también tener en cuenta lógicamente la difusión y aquí entra un problema que

con medios como berria tenemos que es medir la difusión entonces bien sea por venta

por medidas que hay organismos que miden la difusión ese dato el gobierno vasco debe tenerlo y debe de exigir que se le aporte más difícil es en medios locales gratuitos

para terminar y en este sentido quiero decir que es fundamental dejar claro que esto no es una confrontación entre medios de ámbito general

como de ámbito territorial y medios locales

cada uno tiene su papel y simplemente son distintos cualitativamente entonces en este sentido quizá si convendría que desde las administraciones públicas especialmente en este caso

fomentara la concentración dentro de lo posible de los medios locales para que ganaran peso y capacidad de difusión por ejemplo en el alto deba han fusionado medios y han creado

que es un buen camino a seguir para terminar felicitarme de nuevo por este acuerdo y pedir a todos

llevamos treinta y cinco años a favor del euskera aquí no hay ningún dislate se pide al gobierno que de acuerdo con criterios razonables revise

muchas gracias señora presidenta señorías estamos ante un debate falso tramposo se han puesto ustedes de acuerdo

realmente que quiere ocultar un debate de fondo que es el reparto de la pasta en relación con el euskera este debate viene de un debate previo en los medios de comunicación en las instituciones lo trae bildu que lleva acusando al gobierno vasco

menospreciar y castigar al euskera porque se ha reducido

berria que recibe de subvenciones más de dos millónes de euros al año quién fiscaliza esto el gobierno vasco

euros le regala un millón trescientos mil y el debate del euskera siempre se plantea en estos términos

o se ataca al euskera dice bildu si desapareciera berria

se quedaría sin periódico usted cree que berria es una referencia para toda la comunidad hablante del euskera

pensamos que no usted cree que se puede decir en relación con el reparto de la pasta hace unas semanas se cerró la causa económica de egunkaria ahora el gobierno vasco inicia una nueva causa económica esta vez contra berria pero no queda aquí el pnv lleva acusando de repartir porque esta acusación de bildu que le quitan a berria para dárselo a otros pero el dinero a los medios del euskera no ha bajado es el mismo

euros no se ha reducido el pnv ha decidido darle menos a berria para darle más a no sé quién pero es que el pnv

reparte la pasta a los medios afines y da más a los que les interesa a los afines discrimina a unos medios para beneficiar a los afines denuncia el pnv en gipuzkoa y en el ayuntamiento de san sebastián los peneuvistas dicen los medios manejan informes que reflejan una distribución de las subvenciones del euskera alejadas de lo que marca la norma foral oiga pero ustedes qué están haciendo

como excusa para repartir dinero a los medios a los que les interesa al pnv en unos casos a los que interesa a bildu en otros casos

para eso el euskera como excusa como vienen utilizando muchos de ustedes el euskera como excusa

de otro debate y el psoe en este caso de comparsa porque no se atreve a plantear

el fondo de esta cuestión es que aquí se están repartiendo la pasta los negocios de los amigos solo de los nacionalistas y utilizan el euskera como una excusa

escrito en euskera que sea público no le tenemos que estar regalando el dinero de los impuestos de los vascos a ninguna empresa privada si hace falta

que e i te be ponga en marcha un diario escrito público que trate de respetar la pluralidad de esta sociedad y que podamos fiscalizar oiga

el gobierno vasco le da un millón cuatrocientos mil a berria le da a gara al otro al no sé qué oiga pero es que la diputación de gipuzkoa también reparte a esos medios uno millón

pero es que el ayuntamiento de san sebastián oiga gobernado por bildu es que a gara

le da el doble que al diario vasco el doble así con sus bemoles

y luego con la excusa del euskera repartimos aquí a los negocietes claro así luego tenemos cuarenta y siete troles que me insultan a mí por las mañanas y cuando veo quienes son pues trabajan uno en berria el otro en gara

para hacer oposición de la oposición esto es una vergüenza

para subvencionar a medios que están al servicio de la estrategia de la izquierda abertzale o del nacionalismo en general

si ustedes tuviesen si ustedes tuviesen la decencia de trabajar por el euskera se preocuparían muy mucho que los medios que deben de ser referencia

fuesen medios plurales fuesen medios con los que se puede identificar una mayoría de esta sociedad no medios sectarios no medios al servicio de estrategias políticas eso es trabajar en contra del euskera señores eso es trabajar en contra del euskera y no tenemos que pagar con el impuesto de todos

ni los chiringuitos de sus amigos y ese es el debate de fondo de esta cuestión porque corrupción corrupción en el país vasco en euskadi la corrupción se llama clientelismo subvencionar chiringuitos de los amiguetes se llama subvencionar negocietes

el euskera y otras muchas que podemos compartir pero desde luego lo que no compartimos es los medios con los que ustedes pretenden explicarnos encima que llevan no sé qué banderas en defensa de nuestra lengua

que el partido socialista una vez más trague con ruedas de molinos que hable

el dinero que reciben determinados medios es un escándalo que algunos pretendan vivir del euskera no para el euskera

ni vive por el euskera ni trabaja por el euskera el euskera se lo pasan por el arco del triunfo

como modus superandi modus vivendi de sus propias estrategias políticas y eso es una vergüenza

eskerrik asko presidente andrea señor oyarzabal tengo que reconocer que es usted coherente no con su trayectoria ni con lo que ha defendido en este parlamento que yo he oído muchas veces su partido respecto al euskera al menos formalmente que hoy vemos que no era cierto

con la trayectoria que ha tomado su partido en los últimos tiempos de cualquier tema que puede pensar que tiene un pequeño reflejo electoral en una pequeña bolsa de población cuando ve un titular y recurrir a él de una forma casi casi mezquina la agresividad que ha mostrado usted con el partido socialista en la tribuna y si no

la agresividad que ha mostrado contra el partido socialista no tiene

fin no son precisamente apreciaciones lógicas sobre algo que yo he explicado

del respeto al euskera del apoyo a la promoción del euskera de la defensa del consenso con el euskera

porque lo que ha dicho ha sido un mensaje y perdóneme burdo

ha mezclado churras con merinas porque por un lado no hay más dinero en esta convocatoria

del que había hace dos años o tres y usted no protestaba entonces sin embargo hoy protesta por la cantidad no puedo entenderlo no puedo entenderlo si hay cuestiones de reparto distinto denúncielas pero ahí ni están en la convocatoria de hoy ni yo conozco ni es responsable el partido

interesa mezclar para buscar algún titular

electorales por la desesperación yo le emplazo

yo le emplazo a que venga a discutir sobre el euskera que diga

dos es criticable ahora el cambio es criticable nosotros lo hemos puesto sobre la mesa y hemos buscado un acuerdo para que esa modificación se haga de acuerdo con el criterio de pluralidad de la sociedad vasca que es exigible

a cualquier medio de comunicación que reciba fondos públicos y hay que exigirlo

pero estamos hablando de la política lingüística y si tiene que haber medios que por publicarse en euskera tienen que tener una ayuda y fíjese yo no soy precisamente un defensor de berria per se creo que debería de haber y esforzarnos todos en que haya más medios de comunicación

en euskera pero la financiación pública de berria pública total en papel está en torno al veinte por ciento el otro ochenta unos dicen diecinueve otros el veintiuno el otro ochenta por ciento aproximadamente no es financiación pero eso es independiente la cuestión es que el planteamiento que ha hecho usted contra la actitud del partido socialista hoy aquí contra la transacción que hemos acordado va en la línea

en contra como un obús a lo que usted ha dicho defender y su partido durante treinta años que es un consenso lingüístico básico y no es cierto porque

lo que se discute hoy que hay que mejorar estaba hace dos

todas las administraciones públicas vascas conceden subvenciones a los medios de comunicación en euskera porque

son instrumentos para la normalización lingüística entonces no son ongs son empresas entonces si no tiene

yo le solicitaría que no emplee esas palabras no son negocietes no son chiringuitos son empresas o proyectos que compiten en libre concurrencia a una convocatoria

con un jurado con unos criterios etcétera isasi jauna agerraldian esandakoak irakurri ditut

hoy centrado en el apoyo o no al euskera estamos hablando de las subvenciones subvenciones a los medios del euskera y hemos estado asistiendo

que debe ser que hasta hoy no les ha interesado llegar a acuerdos utilizar un tono comedido porque le he leído algunas cosas de los medios de comunicación

de utilizar las subvenciones a su conveniencia de utilizar las subvenciones del euskera para favorecer a los amigos bildu le acusaba de eso al pnv y el pnv le ha acusado de eso a bildu en gipuzkoa luego

los que han estado dando por bueno que realmente ustedes están utilizando las subvenciones del euskera para lo que les da la gana no para promocionar el euskera sino para otras cosas señor isasi el problema no es si yo

de quien no lo conoce el problema es que aquí ya en euskadi hay

al trágala de tener que utilizar berria u otros medios como medios de cabecera mire si el único medio en castellano

se lo puedo asegurar o sea la comunidad lingüística del euskera no está dispuesta a que sus referencias sean

a que ustedes utilicen la lengua y los medios del euskera para su estrategia política esto es una vergüenza para el país ustedes son los que realmente ponen palos en la rueda

ustedes son con su sectarismo los que ponen palos en las ruedas y señor reyes sinceramente nosotros hemos denunciado estas cosas desde hace ya mucho tiempo hemos criticado siempre

con la materia lingüística y también cuando ustedes gobernaban lo hacíamos hubiesemos cambiado las cosas

no estamos cautivos de nuestra responsabilidad como socios de los gobiernos nacionalistas durante tantos años ni estamos cautivos ni tenemos complejos en denunciar lo que nos parece un abuso un escándalo auténtico y cuando ustedes gobernaban nosotros tuvimos la deferencia

de apoyarles con total lealtad de apoyarles para que ustedes cambiasen algunas cosas

pero nosotros aún y todo persistimos en darles el apoyo con total lealtad con total generosidad pero ustedes

a asumir el discurso único que nos tratan de imponer estos señores nacionalistas y eso es lo que a mí me da pena señor reyes

que es una vergüenza que tengamos que asumir aquí como debate razonable el pataleo de unos nacionalistas contra otros para ver quién se lleva la pasta aquí

no quiero entrar por eso he venido aquí a denunciar que este era un debate tramposo donde no hay reducción de las ayudas al euskera ni nosotros hemos criticado que se aumente o se deje de aumentar no es la misma partida cuatro millónes ochocientos setenta y cinco mil euros

y sobre la misma partida el gobierno nacionalista ha decidido variar

exactamente por lo que denuncia el pnv lo mismo ha hecho bildu en gipuzkoa que ha decidido favorecer más a gara y a berria

las instituciones guipuzcoanas mira en ese cambalache de a quién apoyo más a mis amiguetes y a quién mantenemos con dinero público durante

para que se dediquen desde sus páginas no ha promocionar el euskera ni la pluralidad de nuestro país sino a machacarnos a los que no somos nacionalistas

es una vergüenza y usted decía antes que el dinero público a los medios de comunicación como mínimo además de poder fiscalizarse

respeto al pluralismo y respeto a la verdad y no que se utilicen los medios de comunicación para utilizarlos al servicio de estrategias políticas

es una vergüenza que tenemos que denunciar eskerrik asko oyarzabal jauna eztabaida amaituta

egun on guztioi eta ongi etorria euskal irratiko langileei los socialistas presentamos esta iniciativa instando la dimisión de la directora general de e i te be porque pensamos que la radio televisión vasca como servicio público no responde a los intereses generales de la ciudadanía vasca no cumple con los principios de pluralidad

mantiene un a postura y lenguaje ambiguos respecto del terrorismo y de la defensa de los valores democráticos los socialistas creemos que la actual dirección de e i te be

en un medio de propaganda del gobierno del pnv y en un agente activo de proselitismo nacionalista esto es lo que ha ocurrido en el año y medio de gestión de una directora general que pretende descargar la responsabilidad de esta deriva editorial sobre la espalda de los trabajadores la responsabilidad es de quienes dirigen el ente y de quienes

los distintos puntos de vista que existen en una sociedad democrática sobre cualquier materia deben verse reflejados en los medios en sus diferentes líneas editoriales cuya función social de garantía de pluralidad está definida en la constitución pero cuando hablamos de un medio público como e i te be

con el sentido y objetivos que vienen definidos en la ley por la que se creo el ente los socialistas acordamos que se siguiera cumpliendo con esos principios esa fue la razón y no otra

a quien el gobierno había propuesto para dirigir la casa porque hubo un compromiso del gobierno nosotros dimos el paso hoy quiero ratificar

los socialistas queremos una e i te be que defiende y promocione los valores cívicos de la convivencia reconocidos en la constitución y en el estatuto de autonomía en defensa del interés general así como los derechos amparados por ambas normas especialmente los de la tolerancia la convivencia de todos y el respeto al pluralismo político religiosos social

a los seis meses la confianza que habíamos manifestado con nuestro voto comenzó a quebrarse comenzamos a comprobar que los informativos se cambiaban lenguajes

se cambiaba el mapa del tiempo y comenzamos a manifestar opiniones críticas sobre estas cuestiones que incidían directamente en la línea editorial

fue la presentación del plan estratégico que nosotros mismos habíamos promovido

que introducía las medidas a adoptar por el plan se mencionaban aspectos económicos políticos y sociales que desde una perspectiva histórica y social incidían en la situación actual pero no se hacía mención alguna a la situación de violencia terrorista que había vivido euskadi la dirección no reconoció el error y tuvimos que tomar la incitaba para remediarlo

la manifestación de que ni la dirección ni el gobierno vasco querían entender cuál era la realidad quedó claro que no iban a respetar el espíritu y el acuerdo que había facilitado la elección de la directora general no lo quisieron entender y optaron por lo contrario se optó por la huída hacia adelante prescindiendo de los apoyos de quienes permitimos

la directora general desestimó cuantas sugerencias y aportaciones se le realizaban tanto a través del consejo de administración como en conversaciones directas las alertas que se le trasladaban sobre la línea editorial las audiencias las relaciones laborales

esta actitud se vio perfectamente reflejada en diferentes comparecencias y respuestas

como a la consejera en octubre de dos mil trece y febrero de dos mil catorce quedó patente que no se quería enmendar la línea emprendida

por eso en marzo de este año retiramos públicamente el apoyo a la directora general habíamos dicho reiteradamente que nuestro voto de confianza no era un cheque en blanco para que se pudiera hacer con e i te be lo que le viniera en gana a la dirección

que la directora no quería restablecer la confianza con quienes le habíamos apoyado en su nombramiento y sin embargo demostró

que desde nuestro punto de vista seguían alejándose

se aprobó en abril de este año por el consejo de administración una ope

lo que supone en realidad es un ere encubierto la desaparición de treinta empleos públicos que entre otras cosas

a los aspirantes a esa ope una ope que está resultando todo un hito en la historia de e i te be una ope que ha provocado el conflicto social más importante de su historia una ope que está recurrida una ope que no se sabe cómo acabará

que va a tener un gran coste humano y económico la actitud con respecto a la ope ha sido una muestra más

no negociar con quienes habían mostrado una actitud abierta y dialogante y habían apoyado su elección y sin embargo en correspondencia con las decisiones que se estaban tomando en línea editorial y contenido de e i te be una vez más la directora general

la directora eligió ese modelo y eligió concertarlo en eh bildu

y el gobierno vasco quienes tienen que asumir las responsabilidades de la situación

de poco le ha servido a la dirección de e i te be esta actitud condescendiente con otros hace pocos días constatábamos en esta misma cámara que al menos en el discurso público ningún grupo de esta cámara salvo el pnv comparte la gestión de esta directora

y estos con matices si nos fijamos en la enmienda que han presentado a esta iniciativa

si una directora que debe de ser elegida con mayoría absoluta de la cámara hoy solo cuenta con un tercio debe dimitir la dirección no es capaz de alcanzar mayorías politiza su gestión y no asume la capacidad de control que tiene este parlamento sobre su actuación

que vean no ya los problemas de contenidos sino su propia incompetencia para la gestión económica y de recursos humanos no coincidimos con la línea editorial que está llevando a cabo la actual dirección estamos por ejemplo en contra de que se utilice un lenguaje ambiguo

y debates se trata de presos vascos a quienes están condenados por delito de terrorismo la tendencia a tratar de explicar lo que ha ocurrido en los últimos años en este país como consecuencia del conflicto vasco así como tampoco aprobamos la pésima gestión de los recursos se olvida el carácter de servicio público que tiene e i te be y se pretende competir con los medios privados apelando siempre a mejorar la capacidad financiera a cuenta del erario público por supuesto a cuenta de que cada familia vasca de cuatro miembros por ejemplo aporte más de los actuales doscientos

anuales doscientos euros que no se devuelven a las familias en concepto de servicio público de calidad informativa no se devuelven y no podrán devolverse mientras en la línea editorial

una parte de la población bien por problemas laborales por ausencia de un modelo audiovisual y de programación una parte sustancial de la población no sintoniza con e i te be

queremos además que el gobierno proponga una alternativa en un mes porque este es un problema del gobierno lo dijimos en marzo de este año y lo trasladamos hoy a consideración de este pleno

y optamos por facilitar la gestión del ente sobre unos principios que hoy no se cumple o cuenta con otros aliados o debe impulsar el cese de quien designó

acordó la defensa de lo que dice la ley de creación del ente el gobierno está en su derecho de certificar que tiene otros intereses para e i te be

no contará con nuestro apoyo eso es lo que debe quedar claro en esta sesión para que nadie se lleve a engaño o mejor para que nadie por nuestra parte los socialistas reiteramos nuestra defensa de un servicio público de radio televisión y un servicio público debe tener como finalidad última la de crear un instrumento objetivo plural veraz y de calidad porque eso significará que el dinero que los ciudadanos gastan en el mismo tiene

sobre todo de los medios de televisión bajan las audiencias de manera clara e te be uno no consigue ser un referente ni de lejos para los euskaldunes

con uno de sus cometidos fundamentales como es el impulso del euskera la ciudadanía vasca está suspendiendo día a día a la actual dirección datos recientemente publicados

que e te be uno tuvo un cero coma siete por ciento de audiencia y e te be dos un siete coma ocho por ciento de audiencia

no es solo sumar personas es también saber qué personas están ante el televisor o por qué se eligen otras opciones hay que sumar personas e ideas

suman solo a una parte de esta sociedad muy respetable pero limitada esa es la realidad que no se puede enmascarar con estadísticas lo mismo que la suma de minutos de presencia de cada partido no refleja la pluralidad cada partido llevamos nuestra agenda la de los socialistas no tiene que ver con la de los nacionalistas apenas dedicamos tiempo a perdernos en debates soberanistas

y nuestra presencia en e i te be se reduce a la opinión que damos sobre la agenda de otros ese es el problema de fondo los nacionalistas quieren imponer su agenda y temario

resaltando lo que a ellos les interesa casi siempre para tapar

han convertido a e i te be en la caja de resonancia de lo que ellos y solo a ellos les interesa

una herramienta manipulada y mangoneada a su gusto por otra parte la tergiversación de los números no va a convertirse en el velo con el que ocultar la realidad ni los datos interesados y parciales de audiencia ni la medición del tiempo dedicado a cada partido

no valen los números sin explicación nos importan más los principios

o que fueron expresamente pactados con los socialistas para hacer posible su nombramiento y creemos que ha decidido poner en riesgo la estabilidad y la sostenibilidad de la radio televisión de todos los vascos

en una aventura buscando aliados coyunturales a cambio de una agenda netamente nacionalista pero que en el fondo solo responde a sus intereses a los del propio partido que sostiene al gobierno

si comparte esta aventura que no tiene nada que ver con la defensa de un servicio público de radio televisión

por de pronto si hoy no cuenta con la mayoría absoluta que respalde su gestión la directora general debe dimitir y sí está en su mano es verbo reflexivo dimitir en manos de cada uno nadie puede dimitir por uno es una actitud personal hoy también comprobaremos si ciertos discursos críticos son sinceros o si por el contrario

que no está respondiendo a los intereses de la mayoría de la sociedad y que arrincona principalmente a los euskaldunes en cualquier caso estamos seguros

no puede convencer más a quienes pretendan aprovecharse de un bien común para beneficio propio hemos firmado una enmienda con el proponente de la moción

upyd y con el grupo popular que también enmendó la proposición que nosotros hacíamos

que resume todas las ideas que he venido manifestando y que para

en el tercer punto hay una repetición de

se corregirá porque ya le hemos dicho a los servicios de la cámara que lo corrijan a la hora de llevar

presidenta como decía el señor unzalu hemos llegado a una transaccional con el grupo socialista y con el grupo para pedir la dimisión de la actual directora general de e i te be por incumplimiento reiterado de la función que la ley le asigna por incumplir

en esta ley y proponemos instar al gobierno vasco a que en el plazo de un mes someta a consideración de la cámara una nueva candidatura para ejercer la dirección general de e i te be e instamos también al gobierno vasco a que el candidato o candidata a director o directora general de e i te be con el fin de garantizar

e i te be preste un servicio público de calidad objetivo veraz e imparcial al servicio de la ciudadanía vasca un programa de actuación en el que se reflejen los contenidos de la programación del ente y en especial el de los programas informativos y los de debate que se comprometa a defender señoras y señores parlamentarios señor lehendakari saben ustedes cuáles son las funciones que deben cumplir los medios públicos de comunicación objetividad informativa

respeto al pluralismo político veracidad en los hechos que se cuentan señoras y señores parlamentarios señor lehendakari ustedes piensan

dirección de e i te be la actual e i te be dirigida por la señora iturbe cumple las funciones para las que se supone que existe nosotros pensamos

la viene demostrando durante el año y medio que lleva dirigiendo el ente público todo lo contrario la actual e i te be es un claro

al servicio de los intereses del partido nacionalista vasco y del gobierno vasco con el dinero de todos los ciudadanos un instrumento para defender

egiatasuna printzipio hauek ez ditu betetzen históricamente ya sabemos qué ha pretendido ser y qué ha sido e i te be

nacionalista para nacionalistas y qué es hoy también lo sabemos perfectamente un ente que tiene como objetivo

a los ciudadanos vascos en nacionalistas que traslada una visión parcial y parcelada de la sociedad vasca que informa de manera profundamente

al interés general del conjunto de la sociedad lo llevamos denunciando años y especialmente lo llevamos denunciando en el último año y medio porque en todo este tiempo todo ha ido a peor y no estamos dispuestos a asumir

que nuestro dinero el dinero del conjunto de los ciudadanos se utilice para beneficiar al partido nacionalista vasco o

hablamos de muchas cuestiones que se acumulan

con el sur de francia y navarra incluidos para trasladar que vascos navarros y ciudadanos del sur formamos parte de una misma comunidad política hablamos de los informativos convertidos en monográficos de la causa nacionalista de la causa y el programa nacionalista con permanentes informaciones relativas a presos de eta a la política penitenciaria de los presos de eta a actos y actividades

a la temática nacionalista al conflicto político entre comillas a la versión nacionalista y tramposa del derecho a decidir y al programa político nacionalista en definitiva incluidas informaciones relativas a lo que ocurre en navarra o en el sur de francia en esos lugares no ocurra nada relevante que interese a los ciudadanos que financiamos e i te be aunque no ocurra nada relevante siempre hay que incluir algo relativo al sur de francia y a navarra para trasladar esa idea de que vascos ciudadanos del sur de francia y navarros formamos parte de una misma comunidad política y todo esto mientras se oculta

o se reduce la información que pueda perjudicar al partido nacionalista vasco determinados temas no existen en e i te be podemos hablar

de ibar zaharra podemos hablar de la publicidad institucional y legal puesta en marcha por el gobierno o de tantas otras cuestiones cualquier cuestión que perjudique los intereses del partido nacionalista vasco o del gobierno

aparece en e i te be desaparece o se reduce a la mínima expresión bien sea la crisis económica responsabilidad de este gobierno bien sean los recortes sociales y tantas otras cuestiones que pudieran perjudicar

nacionalista vasco respecto a los programas de debate tertulias y demás exactamente lo mismo o peor los presentadores no son presentadores son nacionalistas que realizan una presentación de los hechos absolutamente nacionalista los moderadores no son moderadores son nacionalistas que

en los debates que se desarrollan en e i te be como un miembro más del partido nacionalista vasco o como un nacionalista más dispuesto a también realizar sus aportaciones evidentemente no estamos hablando solo de la distribución de los tiempos o la temática sobre la que

son los tiempos es la temática es cómo se tratan los temas

es el modo de contar lo que se cuenta son los presentadores son los moderadores entre comillas son las preguntas que se realizan en los debates

en fin convertidas muchas de ellas en prácticamente monólogos de los representantes del partido nacionalista vasco y en algún caso también de eh bildu ya no hay ni disimulo es el modo son las maneras es en definitiva todo y todo evidencia una estrategia

la causa nacionalista con dinero público en la e i te be españa es un país extranjero y el estado español un estado opresor cuando

a los vascos solo nos representan o el partido nacionalista vasco o amaiur únicos partidos vascos según las mentes preclaras de e i te be

de las víctimas del terrorismo ni existen ellas ni existen sus reivindicaciones ni sus actos o actuaciones todo en última instancia

creo que compartimos incluso todos los grupos de la oposición todo

aldatu behar dugu eta horregatik iturberen dimisioa eskatzen dugu la oposición en pleno ha criticado en los últimos tiempos de manera

nítida y perfectamente clara la gestión y las decisiones de la actual directora general de e i te be se ha hablado de manipulación informativa

de adoctrinamiento de nodo de proyecto e instrumento

de sectarismo de líneas rojas que han sido trasladadas y sobrepasadas durante todos estos meses se ha hablado y se ha dicho que e i te be está al servicio del partido nacionalista vasco la señora iturbe compareció además en la comisión de control de e i te be

podemos recordar perfectamente que la señora iturbe faltó el respeto a los grupos de la oposición que despreció a los grupos de la oposición que evidenció una ausencia absoluta de autocrítica y que mostró

prepotencia la señora iturbe por lo tanto debe irse ya

cuanto antes por sectaria y por estar al servicio del partido nacionalista vasco y del gobierno vasco y del conjunto del nacionalismo no tiene ya

ni un minuto más y por lo tanto pedimos su dimisión inmediata gracias eskerrik asko maneiro jauna

y es la comparecencia que la directora de e i te be tuvo en esta cámara el pasado mes de octubre una comparecencia que había pedido este grupo en junio a fin de que diera cuenta

y de los programas de debate como decía esta comparecencia se sustanció en octubre pero a pesar de haber trascurrido varios meses lejos de perder fundamento

el trascurso del tiempo le había dado más vigencia si cabe y desde que la comparecencia tuvo lugar hasta este momento

como dije cuando se sustanció la comparecencia y como otros se han puesto hoy de manifiesto aquí de todos los medios públicos lo que se debe esperar es que se recojan los criterios de imparcialidad

por tanto pusimos de manifiesto que lo que cabe esperar de e i te be como televisión pública que se paga con los impuestos de todos los vascos

cualquiera que sea nuestra ideología nos sintamos representados que sea un medio de comunicación

esos principios que aparecen en la ley de creación del ente de que debe prestar un servicio de calidad objetivo veraz e imparcial al servicio de la ciudadanía vasca

porque e i te be el servicio prestado por e i te be ni es objetivo ni es imparcial ni responde a los intereses de todos los vascos según datos como dije en esa comparecencia según datos del último sociómetro vasco los problemas ligados al mercado de trabajo y los problemas económicos

los dos primeros puestos entre la problemática que acucia a los vascos pues bien bastante más abajo en esas preocupaciones de los ciudadanos vascos están

o el estatus político o cataluña que está omnipresente en la parrilla del ente pero para e i te be aquello que es de interés para los ciudadanos

pagan este medio no es un criterio a tener en cuenta a la hora de fijar los contenidos y esto lejos de ser negado por la directora de e i te be fue corroborado por la misma que señaló que no se tenía que tener en cuenta el sociómetro sino que los contenidos de los debates o de los informativos debían de responder a otros criterios

y esos son o bien hacer de propaganda al gobierno o bien seguir la agenda marcada por los intereses de los partidos nacionalistas que como una campaña

sino la publicidad de los intereses nacionalistas que el criterio a seguir es siempre el mantenimiento de la burbuja nacionalista porque es mantenerse en esa burbuja la que perfila la programación y los temas de actualidad en e i te be

a los temas que interesan al gobierno sí pero también a los grupos nacionalistas al pnv y a bildu por eso

el nuevo modelo de estado el acuerdo con madrid el estatus del país vasco los presos de eta

y son lo que forman la mayoría de los informativos de la cadena en todos los informativos en todos los programas de radio euskadi de e te be uno de e te be dos las iniciativas parlamentarias de pnv las acciones del gobierno se convierten de forma habitual en referencia obligada para los contenidos de información y debate estos siempre están en la escaleta

de las iniciativas de otros grupos esas son obviadas como se decía aquí existen realidades en este parlamento vasco que nunca tienen o tienen un escaso eco en e i te be

pero eso sí si hablamos de comisiones de investigación en navarra entonces encuentra un gran altavoz en la radio y televisión pública vasca

es decir aquellos que puedan salpicar a quien aquí gobierna o bien van a la cola de los informativos o directamente jamás son tratados a iniciativa de la cadena

despliegues sin precedentes en la cobertura del gure esku dago que lo que únicamente tiene como objetivo es apostar por el derecho a decidir y por la independencia

el que vivimos el nueve de noviembre en cataluña al que se le dio un tratamiento como si el hubiera llegado a la luna por primera vez etb desde el viernes hasta el lunes trasladó allí un equipo con lo que ello supone además de apuesta política concreta de gasto económico pagado con el dinero de todos los vascos eso sí el accidente de autobús en el que murieron

del teleberri suponemos que si el accidente hubiera tenido lugar en iparralde entonces sí

siempre fruto de su visión partidista cómo concibe euskadi la euskadi de los siete territorios a pesar de estar pagada

que formamos la comunidad autónoma de euskadi y esto mismo también podría decirse de los presos de eta tampoco en lo relativo al terrorismo que recordemos que entró en el plan estratégico con calzador porque la actual dirección no quiera meterlo pues también en lo relativo al terrorismo no existe correspondencia y proporcionalidad en el tratamiento mientras el terrorismo del gal con veintisiete víctimas absolutamente condenable pero a ello se dedican monográficos en la televisión y radio vasca

no ocurre lo mismo con el terrorismo de eta con casi mil víctimas

como no se corresponde por ejemplo cuando se lleva a una programa no para entrevistarlos sino para someterlo a un interrogatorio a quien es una persona que ha destacado por aplicar la ley por impartir justicia por hacer frente al terrorismo habiendo sido amenazado con ello

fernando grande marlaska eso sí se lleva a un etarra no arrepentido

sin cuestionarse en ningún momento dicha actitud por quien dirige el programa quizás

las primeras palabras tengan sentido las palabras del primero director de e i te be

como la televisión de este país y lo demostraba por el trato preferente que nos daban al otro lado de los pirineos y en las cárceles para conseguir información

desde el pp nos preocupaba muchísimo esa utilización

siempre de los mismos temas y así lo pusimos de manifiesto en la comisión porque vemos que se está produciendo y lo quiero volver a repetir aquí un divorcio entre la sociedad vasca que cada día se ve menos reflejada en los contenidos de la cadena y ello se demuestra en las audiencias en las audiencias teníamos la última de octubre ha aparecido son cada vez menores no se ve reflejado en los contenidos de la cadena porque

suplantado a las preocupaciones reales de los vascos dentro de los contenidos informativos o debate porque cuándo aparece la acción o mejor dicho la inacción

nunca en los programas talk show de la cadena los temas son siempre recurrentes y siempre en relación a una temática política en favor de un determinado espectro político

en cambio el tratamiento de asunto relativos a otros partidos no nacionalistas siempre son tratados desde la crítica y en numerosas ocasiones sin contra argumentaciones

insultan y calumnian libremente a personas y cargos públicos sin ningún fundamento siempre casualmente estos cargos públicos del mismo espectro político

decía aquí lejos de reconducir el debate o los jalean o participan en la misma crítica rebajando así la calidad y alejándose de la imagen de lo que debe tener

es necesario recordar que el objeto de cualquier medio de comunicación es informar y no adoctrinar

con el dinero de todos los vascos que por cierto dinero que cada vez es mayor porque dado que los ingresos por publicidad bajan tenemos que estar compensando desde el gobierno vasco esa disminución de ingresos

y si mostrábamos nuestra preocupación antes de la comparecencia de la directora después de esa comparecencia ya no solamente estábamos preocupados sino que veíamos con estupor cuál fue su contestación porque fue absolutamente desproporcional y desde luego no correspondía con quien está

no solo manifestó como decía antes que el sociómetro no debe ser un criterio que debiera seguirse para elaborar los contenidos de los telediarios y los programas de debates con

nos atacó especialmente a este partido la consejera el otro día señaló en el pleno que eran errores puntuales no es así no son errores puntuales es una forma de proceder es una forma de dirigir e i te be y ese es el problema

nosotros habíamos presentado una iniciativa que luego se ha incorporado a la enmienda de transacción

dada la postura que el otro día adoptó en la comisión como décimos atacando a los grupos de la oposición y entrando en el debate político como si un miembro del grupo nacionalista más se tratara

pasa por un replanteamiento de los contenidos de e i te be un replanteamiento de lo que debe ser e i te be que recupere

y no que haga lo que su primer director al que me voy a volver a referir quería que era

una televisión abertzale para abertzales y después